bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea el acuerdo el que

es un buen acuerdo señor maroto del que ustedes se quedan fuera habla del límite patrimonial de que todos nos hemos equivocado y que

la enmienda en ningún momento se habla de límite patrimonial se habla de falta de liquidez lo primero y como le ha dicho la señora blanco también

y los múltiples y reiterados recortes que vienen impulsados por el gobierno del señor mariano rajoy utilizando esa mayoría absoluta que tiene esos recortes que han

que tenga nuevas necesidades y demandas y que entonces se le está pidiendo al gobierno que examine esas demandas y nuevas necesidades que esa crisis y esos recortes han producido para que de esa forma

el decreto y dar cobertura a estas personas que lo están pasando francamente mal eso en primer lugar en segundo una vez más usted ha bajado aquí como también le decía la representante de bildu a hablar de su libro que como últimamente pues desde este pasado verano ha cogido el tema este de las aes y de la rgi etcétera y lo está convirtiendo

electoral pues ha empezado a hablarnos de esa famosa ilp que está impulsando y que todavía aquí no tenemos conocimiento de la misma

y como usted hablaba de rectificar y de cuando se equivoca pues creo que lo que debe hacer es aplicarse el cuento y rectificar porque desde luego en este caso

y el resto de esta cámara estemos llegando a acuerdos totalmente en contra de sus posturas

hablaba

las ayudas de emergencia social que le recuerdo que son en su conjunto ambas

ese sistema de protección social único y son un conjunto el sistema de protección con el que nos hemos dotado en este país desde hace

está intentando por activa y por pasiva romper de mil y una maneras

canales como les llamaba usted se le ha olvidado también hacer mención a la diferencia que hay entre ellos

la rgi y la pcv son derechos subjetivos y las tienen naturaleza subvencional como usted bien sabe pero esto por si acaso no lo ha mencionado cuando nos estaba dando la clase de las diferencias entre los dos canales

y por último también otro detalle que no ha mencionado que es el decreto en vigor regulador de las aes el cuatro barra dos mil once

once punto dos habla de la obligación

los ayuntamientos de minorar la cantidad que el gobierno les entrega para

obligación es imperativo el artículo

que a ver quien estaba gobernando con ayuda de quien fue aprobado en dos mil once y es imperativo

en septiembre la de septiembre a pesar de que pueda tener mayores necesidades se quede sin la ayuda de las aes porque usted no ha hecho la minoración a la que está obligado por ese

y para finalizar simplemente decirle que el acuerdo alcanzado hoy es bueno

y estamos dispuestos a ver y a analizar esas nuevas necesidades y demandas que han surgido como consecuencia de la larga crisis y de los múltiples recortes que viene desde madrid insisto

y con ello lo que se hará es adecuar ese decreto para que el mayor número de personas posibles puedan tener

para no quedarse fuera del sistema esperemos que pueda también votar a favor porque la verdad con el discurso que ha hecho que ha venido a hablar de lo suyo

podría perfectamente votar a favor de la enmienda transaccional alcanzada por el resto de los grupos

la última intervención ha sido del todo reveladora

minoren ustedes las cantidades a todos los perceptores de ayudas de emergencia social lo que hay que hacer la solución del pnv es minoren ustedes las cantidades

vamos a tener menos cada mes para las necesidades habituales esta propuesta que ustedes plantean hoy es con la misma cantidad económica en el presupuesto de las aes con la misma cantidad

vamos a aumentar el número de personas que deben cobrar las ayudas de emergencia social y la respuesta

y los alcaldes lo que tiene que hacer es minorar las cantidades minorar las cantidades cuando salga de aquí y me encuentre una persona en la calle y me diga

se ha aprobado una iniciativa para que las personas que no tenemos liquidez entre otras cosas cuando tienen un patrimonio adicional

me he enterado que en el parlamento el psoe bildu y el pnv han aprobado una moción y me van a dar cómo queda esto

lo que me ha dicho el pnv es que hay que minorar las cantidades a todos ósea a mi abuela le tengo que decir te van a dar menos porque ahora con el mismo dinero

digo y lo digo bien claro y lo digo bien alto que esa no es nuestra receta que hay otra fórmula que se llama renta de garantía de ingresos lo que ustedes

que no tiene vuelta atrás que por decir que no a quitar los abusos en las ayudas están diciendo que no también a una propuesta como la que estamos presentando que es a las personas que falta liquidez alas personas que tienen un patrimonio

hay que ponerles una renta de garantía de ingreso que para eso está

o que te minoren o que te pague la cuenta el ayuntamiento de turno porque no tienen recursos su receta es equivocada creo sinceramente y lo digo de corazón porque hay un sentir generalizado en esto fuera de este hemiciclo de que ustedes

que la renta de garantía de ingresos es un sistema bueno que generalmente en la mayoría de los casos llega a quien debe pero que tiene bolsas de fraude y abuso que hay que eliminar por no reconocer eso van a pagar justos por pecadores hoy con su propuesta las personas que necesitan de una mayor cobertura y que ustedes no quieren abrir la puerta de la renta de garantía de ingresos se van a tener que ir a las aes

para que llegue a más yo digo no hay que sumar casos para que llegue a todos y llegue con garantías porque la renta de garantía de ingresos

es un derecho subjetivo el que tiene el derecho lo tiene que tener

es efectivamente de naturaleza subvencional es decir hasta que llega el dinero y si no llega la receta del pnv que ha quedado meridianamente clara hoy aquí

minorar recortar reducir quitar a los que hay ponerles menos dinero porque es la misma cantidad para más gente se han equivocado

porque hay una fórmula alternativa es la renta de garantía de ingresos que es efectivamente un derecho subjetivo

por qué entre los planteamientos de la ilp que tramitamos eso hay muchas cosas pero también está eso y pedimos y lo pedimos honestamente porque hemos hecho una labor de campo como han hecho ustedes si es que me consta que hay muchísima gente del pnv del psoe de bildu o upyd

por qué no a cosas como esta por qué no cambiar el artículo de la renta de garantía de ingresos que ahora dice todos aquellos que tengan patrimonio además de la vivienda habitual fuera

por qué hacen eso por qué no dicen vamos a cambiar la renta de garantía de ingresos y ese artículo que diga ahora se excluyen las personas que tengan

viviendas además de la vivienda habitual o patrimonio de valores de poco valor

por no decir que hay contenidos de esa ilp en la que están de acuerdo por no desdecirse eso no es política

eso es enrocarse como un niño pequeño con el juguete que no me lo quiten que no me lo rompan hoy se aprueba una iniciativa que no es la adecuada

tengan ayudas ustedes han elegido la vía equivocada no es las ayudas sociales que el gobierno vasco corta el grifo en octubre qué les décimos en noviembre

minoren ustedes no hombre no lo que hay que decir es vamos a la ley

hagamos un acuerdo genérico y en lo que estemos de acuerdo avancemos

pero muchas que sí la manera de atajar este problema es como proponemos en esa ilp modificar en la renta de garantía de ingresos esas medidas esto sin dinero es una tomadura de pelo a mucho vascos que se van a creer que mañana
van a tener el problema solucionado muchas gracias eskerrik asko maroto jauna eztabaida amaituta

traigo al parlamento vasco el escándalo que hemos conocido que se ha producido en kutxabank repasemos los hechos que hemos podido conocer

el señor villalabeitia comunicó al consejo de administración de kutxabank

muchos de ustedes que tras una auditoría interna se había detectado

de la misma el resultado de la auditoría interna fue trasladado a los miembros del consejo de administración donde están representados muchos de ustedes en la reunión ordinaria celebrada en la penúltima semana de diciembre en ella

consigue el apoyo necesario para que la documentación fuera remitida al banco de españa para su conocimiento el banco de españa

europeo el caso llega al banco central europeo en enero los responsables de kutxabank muestran al supervisor europeo las pruebas que demostrarían los pagos irregulares autorizados por mario fernández al ex delegado del gobierno socialista en euskadi señor

kutxabank remite a la fiscalía documentación sobre el presunto pago irregular

ex alcalde de portugalete militante socialista y miembro de la ejecutiva

dimite como miembro de la ejecutiva socialista a la que pertenecía

socialista el gobierno vasco muestra inicialmente su sorpresa por la denuncia de kutxabank

desvincula al partido socialista de euskadi de la relación de cabieces con kutxabank y como el partido nacionalista vasco define el escándalo como un asunto privado entre el señor mario fernández y el señor mikel cabieces que no afectaría

ni al partido nacionalista vasco el partido popular también trata de desvincularse y responsabiliza directamente al partido socialista de euskadi y al partido nacionalista vasco

no intervino ningún dirigente del partido socialista de euskadi y añadió que son cuestiones particulares de una relación laboral que debe aclararse en la fiscalía la fiscalía de bizkaia abre diligencias de investigación para comprobar si ha habido irregularidades en kutxabank

analiza la documentación y realiza las primeras diligencias el director de recursos humanos el señor

declaran ante el fiscal hay quien ha afirmado el partido popular y el partido socialista de euskadi

que ayudara a cabieces como consecuencia de ello el ex delegado del gobierno sería contratado durante tres años por el despacho laboralista que trabaja como asesoría externa de kutxabank que lo incorporaría a su equipo y a cambio aumentaría el importe de la iguala mensual que giraba entonces a bbk y semanas más tarde al ya fusionado kutxabank el despacho de rafael alcorta habría aceptado el aumento de su iguala con el banco

a cabieces y afirma que en dos mil doce un líder del partido popular le solicitó una salida laboral para el ex delegado del gobierno y cita casos similares

cabe recordar que el señor mario fernández no solo fue el economista encargado por el partido nacionalista vasco para lograr la fusión de las tres cajas vascas sino que pilotó la negociación política con los principales partidos políticos vascos para alcanzar

kutxa y caja vital cedieran a kutxabank su actividad bancaria

ante la fiscalía habla en ese comunicado de una ley no escrita que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos políticos durante los últimos treinta años en ese comunicado habla de un pacto entre los principales partidos políticos vascos para facilitar una salida laboral a un militante socialista la fiscalía envía el caso al juzgado y pide imputar a fernández cabieces la fiscal ve delito en la operación diseñada por mario fernández para pagar a cabieces estamos hablando de tres posibles delitos de extraordinaria gravedad en nuestra opinión administración desleal apropiación indebida y falsificación de documento mercantil entramos seguramente en lo que es

en nuestra opinión los hechos conocidos nos hacen concluir que estamos ante un asunto turbio que es sobre todo un síntoma que evidencia una forma concreta de hacer política en euskadi por parte de los principales partidos políticos vascos y nosotros queremos que sea y que cosa parecida no vuelva a suceder nunca más auzi ilun baten aurrean gaude gure ustez betiko ate birakariak dira

argitu behar da son en nuestra opinión las puertas giratorias de toda la vida son las prácticas viejas de determinados partidos es el amiguismo y el enchufismo de siempre es la vieja forma de hacer política obviamente no nos creemos y no se lo cree nadie

y alcorta no se lo cree absolutamente nadie hay quien dijo que habría que abrir las ventanas en kutxabank en concreto lo dijo la señora quiroga

hay que despolitizarla y sobre todo limpiar a fondo la política vasca y evitar que casos semejantes puedan volver a ocurrir

por qué los partidos políticos utilizan una institución que no es suya supuestamente en este caso kutxabank para solventar sus problemas qué es eso de leyes no escritas que se saltan la legalidad vigente que sin embargo debe respetar el común de los ciudadanos no estamos por cierto ante una decisión justa como alguno ha pretendido vender sino ante un acto y discriminatorio carente de cobertura jurídica alguna

este caso muestra la forma en que han actuado los partidos políticos durante años en euskadi para repartirse cargos y puestos

preguntamos hay más casos conocen ustedes más casos tienen vía directa con

de cosas parecidas las pueden poner encima de la mesa las quieren hacer públicas se impedirá que puedan producirse casos semejantes en el futuro

y una pregunta que se nos pasa por la cabeza continuamente nadie sabía nada en relación a esta cuestión los principales partidos políticos que estaban ahí dentro

fue un pacto privado o fue un acuerdo entre varios partidos políticos para beneficiar a una persona pero es que ni siquiera es importante este caso concreto no es ni siquiera lo más importante lo más importante es que tenemos que acabar con la vieja forma de hacer política con los pactos secretos con las prebendas

en un determinado lugar es con eso con lo que hay que acabar y lo que nosotros proponemos también en esa moción en euskadi ha habido mucho amiguismo y mucho enchufismo por decirlo claro y no utilizar ninguna palabra que a alguna portavoz del grupo nacionalista vasco no le gusta

me explico todo ha estado repartido y bien repartido son los pactos oscuros para colocar a uno o a otro en diferentes instituciones

había un requisito indispensable tener en regla el carnet del partido político correspondiente esto ustedes me lo pueden negar no lo creo yo creo que lo que deberían hacer por lo tanto es votar a favor de esta moción

por un lado pretendemos que este parlamento apoye la investigación judicial ya abierta de las supuestas irregularidades producidas en kutxabank y alguno me dirá que ese pronunciamiento no

que efectivamente apoya esa investigación judicial porque queremos que se aclare qué es lo que ha ocurrido ahí y también queremos que este parlamento se comprometa a hacer todo lo posible para determinar

que pudieran derivarse de dichas irregularidades y actuaciones no tenemos capacidad suficiente para proponer la puesta en marcha de una comisión de investigación

no ya la puesta en marcha de una comisión de investigación para analizar e investigar este caso concreto sino sobre todo y es lo que proponemos

al menos la puesta en marcha de una comisión de investigación que analizara la forma de comportarse y los pactos habidos que no conocemos entre los diferentes partidos políticos

de esta moción planteamos que este parlamento rechace la utilización de las llamadas puertas giratorias así como el uso por parte de los partidos políticos

órganos reguladores y de control administraciones públicos o sector público societario para defender

pactos secretos y prebendas sus intereses particulares y partidarios en última instancia en fin no se han presentado enmiendas no sé qué

algunos de estos grupos pero en todo caso pensamos que es una moción indispensable muy clara y muy directa

cambiar la forma de hacer política en euskadi y que desde luego este caso concreto

puedan aclararse y acabar en última instancia con esos acuerdos con esos pactos oscuros para repartirse determinados cargos y puestos que han acordado los diferentes partidos políticos durante las últimas décadas nada más y gracias

muchas gracias señora presidenta yo señor maneiro pensaba que nos iba a traer alguna novedad un poco

que nos lea a estas alturas la hemeroteca yo solo le pediría un poco de coherencia es decir si usted le cree

si usted cree a otros créaselos enteros lo que no nos haga aquí es un totum revolutum de aquí cojo esto de aquí cojo esto de aquí cojo esto y entonces creo aquí el lío padre de que todos los partidos los pactos secretos los no pactos secretos

y si hay algún partido que todos los pactos y todos los acuerdos que hace los hace públicos

por escrito y por escrito porque al principio se hacían orales y en fin de algunos te puedes fiar más y de otros menos y entonces al final hace ya bastantes años este partido decidió que casi mejor que cuando se hace un pacto se pone por escrito

que esto también lo hemos vivido como partido político así que desde hace ya muchos años más de ocho le digo a usted que lo hacemos cuando hacemos un pacto lo hacemos por escrito

si es que se puede entendiéndolo como lo habíamos leído no lo que usted nos ha venido aquí a contar y a explicar

desde luego le voy a repetir una pregunta que a usted le hago yo hace ya

no pueden nombrar oiga y quién debe nombrar porque

en época de franco estaba claro franco iba en cadena para abajo

hay elecciones los ciudadanos eligen representantes y luego esos representantes incluso en este parlamento muchas veces elegimos representantes en otros sitios

los representantes de los ciudadanos me quiere usted explicar quién debe hacerlo quién debe representar a los ayuntamientos en otras instituciones

está muy bien esto de decir los partidos políticos tienen que desaparecer oiga disuélvanse ustedes los primeros y a lo mejor les hacemos caso pero claro los demás

y poder gestionar mejor los intereses de los ciudadanos entonces podía haber hecho usted un discurso más coherente

entenderle más lo que está planteando pero si lo que usted ha venido hoy aquí es a plantear que todos los partidos hacemos no sé qué cosas raras y no sé qué pactos secretos

o usted dice que hemos oído oiga yo le puedo decir aquí que yo he oído que alguien de upyd ha planteado algo y es ridículo verdad me lo creo y no me lo creo

claro claro claro pero es que es lo que ha venido usted a hacer aquí alguien ha dicho

esa ha sido su intervención entonces a esto sabemos jugar todos hace mucho tiempo

el partido popular de qué está a favor evidentemente de que ya que está en sede judicial el juzgado actúe cuanto antes

si alguien tiene alguna responsabilidad que depurar y yo qué quiere que le diga es decir cuando alguien está imputado

cualquier juicio por lo que sea cuando menos sus declaraciones hay que ponerlas un poco

derecho a defenderse como estime conveniente otra cosa es que yo creo que se equivoquen algunos o no lohayan hecho muy bien pero de ahí a creernos

si usted va a creerse todo lo que diga alguien que está imputado créaselo entero créaselo entero

lo que no puede venir aquí es a decir en esta parte le creo en esta no le creo

de los partidos políticos este es un tema que todo el mundo

desde el principio está todo investigado en mi opinión con algún exceso de kutxabank porque esto de investigar cuentas corrientes de particulares pues en fin alguno tendrá que explicar eso cómo se hace pero bueno

despacho de abogados que contrata a un señor y a su vez kutxabank

y según kutxabank por no trabajar porque ese es el delito

supuestamente nosotros estamos dispuestos a escuchar y a ver lo que el juzgado decide

y por eso nosotros en su primer punto estábamos dispuestos a apoyar el segundo punto pues como usted entenderá en un totum revolutum que no lleva a ningún sitio

vamos a ver yo no sé lo que entiende usted por puertas giratorias yo entiendo que cuando alguien es abogado pasa por la política cuando termina vuelve a ser abogado y trabajará de abogado y si estaba en banca y pasa por la política pues volverá a la banca

usted no sé qué es lo que entiende no sé qué es lo que entiende por lo de puertas giratorias nosotros entendemos algo

que ya habíamos hecho una enmienda un segundo párrafo pero al final por motivos de

u otros no se ha llegado a materializar pero nosotros lo que sí entendemos es que lo que debe quedar claro es que nadie por haber ejercido un cargo público tiene derecho luego a tener ningún tipo de privilegio en ningún sitio

pretendíamos decirlo nosotros en nuestra enmienda pero por lo que sea no ha llegado en nuestra enmienda y eso hubiera sido nuestro segundo párrafo a y por lo tanto usted decidirá si se puede votar por separado o no
nosotros votaríamos a favor del primer punto eskerrik asko damborenea jauna

presidenta señorías señor maneiro nosotros vamos a votar en contra de su propuesta la ponga entera troceada o como usted quiera
y vamos a votar en contra por tres razones que después

la primera porque aunque reconocemos su tesón por destacar en su práctica antipolítica en esta cámara no le vamos a ayudar no estamos para eso

hace uso de una táctica que es antidemocrática como es acusar de forma generalizada y la tercera porque no aporta nada al esclarecimiento y a la asunción de responsabilidades de las presuntas irregularidades

en su iniciativa en relación a kutxabank mire señor maneiro en mi opinión lo suyo son las piscinas de barro

esto es lo que permanentemente hace usted aquí enfangarse meterse en el barro y querer que juguemos con usted en esa piscina y nuestro problema no es

la trae un día sí y otro también a este parlamento a una cámara de representación de la ciudadanía de producción de leyes y de toma de decisiones y de soluciones a problemas que usted se empeña en depreciar y en despreciar señor maneiro cuando la acción de un parlamentario de un grupo parlamentario guarda un equilibrio

invita a los demás a la consideración y al debate cuando se arrastra en el barro de la mentira de la exageración y de la desproporción

el rechazo frontal señor maneiro usted como yo tenemos protegida nuestra libertad de expresión

en caracterizaciones y valoraciones y usted

afirma y firma que los partidos usamos las cajas de ahorro las fundaciones bancarias los órganos reguladores y de control las administraciones públicas o el sector público societario para defender prebendas intereses particulares y partidarios

provocadora injusta antipolítica solo pueden hacer de una concepción salvadora y defecta

y donde se predica con una verdad y con una ejemplaridad absoluta señor maneiro patético y peligroso

pero sí se lo que he hecho yo y lo que han hecho mis compañeros y compañeras

brevemente luchar por la libertad frente a la dictadura luchar contra el terrorismo frente a eta

sociales en la democracia desarrollar derechos individuales y colectivos intervenir en la redistribución de la riqueza sirviendo a las necesidades colectivas de la ciudadanía favorecer la igualdad perseguir

en cualquiera de sus manifestaciones y algo muy importante poner en pie un estado de derecho para garantizar mediante la acción de la justicia

la protección de los derechos y libertades y la persecución y condena de delitos porque aunque usted todavía no se ha enterado en un estado de derecho

y colectivos su garantía depende de la capacidad de activar la justicia cuando sea necesario

es a esto y en todo esto no ha estado solo el partido socialista pero sí ha estado siempre el partido socialista

ha habido y habrá partidos políticos partidos políticos que como el nuestro hunde sus raíces en tres siglos porque con ello se ha articulado a la sociedad porque con los partidos políticos se han conformado las instituciones

y se ha conseguido una notable organización de la sociedad señor maneiro menos mal que hay pluralismo político en este país que hay convivencia en la diversidad y que el futuro del pluralismo y la convivencia no va a quedar de ninguna manera en sus manos porque

usted solo nos llevaría a su particular fundamentalismo señor maneiro los socialistas nos dedicamos a la noble y edificante tarea de servir a la ciudadanía

y programa a esto y solo a esto nos dedicamos los socialistas y por eso es una infamia y un pretendido insulto la caracterización

que trate con este desprecio al conjunto del socialismo le respondo duro y si tercia estoy dispuesto a responderle más duro todavía los socialistas no estamos exentos de que nuestro nombre

adquirimos en la administración de lo público o desde el poder que en alguna toma de decisión se dispone se puedan cometer irregularidades abusos o delitos no podemos garantizar que nada de esto pueda ocurrir pero no acepto que esto suceda de forma organizada en nuestro partido como usted lo plantea en su iniciativa

de nueve líneas de nueve raquíticas líneas de nueve oportunistas líneas

irregularidades y en la última de intereses particulares y partidarios ya está bien de sus iniciativas de tierra quemada no acepto que partiendo de un caso del caso kutxabank usted arremeta contra todo y contra todos

ya vale de impostar una superioridad moral que nunca ha demostrado desde la ética desde los valores desde los derechos desde la justicia desde la convivencia toda su doctrina no aguanta ni un segundo en pie

acusar a bulto extender sospechas imputar responsabilidades sin demostrar nada es todo lo contrario a la ética a la justicia y al progreso revise hasta las siglas de su partido señor maneiro la justicia en el caso kutxabank ya está activada

está activada y funcionando lo está haciendo desde su independencia lo está haciendo de manera profesional con instrumentos eficaces y sobre esa actuación

porque la justicia para ser justicia para no crear la alarma social y para atender bien a las garantías de un estado de derecho también tiene que ser rápida su moción

de una forma muy suave porque me gustaría decirle cosas todavía más contundentes si quiere hacer un favor a la política si quiere hacer un favor a la organización de la sociedad si quiere hacer un favor de los partidos políticos de la política del parlamentarismo de la vida organizada de la sociedad coja esa iniciativa

iberdrola también tiene acción social tiene obra social lo que pasa que se centra en un sector muy concreto que es de los ex políticos verdad la obra social de las cajas se centra en los ancianos en los jubilados en general

de los partidos políticos que casualmente legislan y actúan a favor de los intereses

parece que había dudas que todavía estamos contando cosas que tenemos la carga de la prueba cuando día tras día

tenemos ejemplos permanentes de políticos que pasan a trabajar en grandes compañías o que pasan a trabajar para grandes compañías o mejor deberíamos decir pasan a cobrar

ya estaban antes durante el ejercicio de su tarea política y eso sí que es una prostitución de la democracia no nos pongamos dignos aquí planteando

al servicio de los trabajadores al servicio de las mayorías sociales y no al servicio de unas pequeñas élites porque sino no se puede entender aquí tenemos

una más pequeña dónde están los ex presidentes de esas fuerzas políticas si queremos hablar de puertas giratorias

gracias a sus méritos ha llegado ya a ser el presidente del lobby petrolero español está en la dirección de repsol eso son puertas giratorias el ex presidente del partido socialista nicolás redondo terreros acabó y tuvo un paso

o acabó en la presidencia de construcciones y contratas o en el consejo de administración por pago a servicios prestados o para engrasar relaciones con no sé qué administraciones políticas antonio basagoiti no se puede decir que haya tenido un paso de la política a la banca más bien es al revés no quiero

y ha retornado al que era su espacio natural cuando se ha cansado ya de tantos jaleos ha levantado el dedo y le han dado un puesto en el banco de un amigo en méxico para vivir como debe vivir y miguel sanz el presidente de navarra

acabó con una dorada jubilación presidiendo bodegas sarría audenasa y demás esto son puertas giratorias bueno se me ha olvidado upyd

todavía no se ha encontrado un medio científico de separar a su presidenta de la poltrona de la que lleva viviendo desde hace veinticinco años y por tanto no llega a tener ex presidente creo que

y aquí tenemos un problema de concepto cuando se denuncia la corrupción o cuando se denuncian las puertas giratorias

hay listas enteras circulando de responsables políticos que ahora se están ocupando

cuando se denuncia eso no son campañas de difamación el problema es que se pierde absolutamente la credibilidad y la ciudadanía pierde la credibilidad en las políticas cuando se encuentra con que los responsables de los ministerios de industria y de energía acaban

sobre las cuales han ejercido su gestión y sobre las cuales han legislado

que han legislado con un ojo puesto en el presente y otro en su futuro en su futuro que se garantizan en este tipo de empresas haciendo políticas dóciles

de estas empresas y eso es la realidad eso es la realidad de la gran mayoría de los partidos políticos precisamente por eso entre otras cosas hay una gran crisis de esa vieja política y hay una necesidad de reflexionar y de cambiar de cambiar esas prácticas entre otras

lecturas absolutamente tergiversadas lecturas políticas absolutamente tergiversadas señor maneiro sobre estos hechos poniendo al pnv en el centro de la diana pero insistimos el partido nacionalista vasco no ha tenido

ni en su origen señor maneiro que no le quepa ninguna duda ni en la actualidad ninguna duda

consecuencia de una decisión personal entre particulares tomada en el ámbito de una entidad privada y usted señor maneiro decía que no se lo cree nadie pues créaselo estamos personal entre particulares tomada en el ámbito de una entidad privada nos reafirmamos en la decisión del pnv de actuar

el resultado de la investigación judicial la posición de kutxabank que cumplía directrices del banco central europeo y la presunción de inocencia

euzko alderdi jeltzalearen irizpideen arabera lan egiten lehen esan duzu los partidos que estaban ahí dentro ahí dentro señor maneiro

banku fundazioen gizarte ekintza mantentzea eta kudeaketa profesionala egitea respetamos la actuación judicial y pedimos respeto para kutxabank que en otro ejemplo de buen funcionamiento

en conocimiento de las autoridades financieras y judiciales berretsi egiten dugu gure legebiltzar taldearen gure konpromisoa kutxabanken proiektua

este es el consejo de administración de kutxabank donde participan el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular

sus propios intereses qué es lo que dice esta moción

o ha hecho como que no entendía lo que proponemos es que este parlamento rechace la utilización de las llamadas puertas giratorias así como el uso por parte de los partidos políticos de todas las instituciones a su alcance para defender sus intereses particulares

defendemos la utilización de esas instituciones por parte de los partidos políticos no he dicho que todas las instituciones sean utilizadas por los partidos políticos pero en todo caso señor txarli prieto esta usted de acuerdo con que esas instituciones

sí o no si vota en contra quiere decir que está a favor de que puedan ser utilizadas como se ha hecho en el pasado por cierto de manera

como en el resto de españa sí estas instituciones muchas de ellas se han utilizado por parte de los partidos políticos por parte de los principales partidos políticos por qué se sienten aludidos ustedes porque efectivamente han estado ahí dentro y han tratado de defender a los suyos

y eso es una realidad de nuevo con la antipolítica con la mentira y con descalificativos semejantes como patético y peligroso por parte del señor txarli prieto y me dice que el partido socialista

a crear y defender el estado de bienestar y me dice que efectivamente eso es el partido socialista ya pero es que también son los ere de andalucía y es filesa

y es bankia y son determinadas comisiones por ejemplo en el ave o es el hundimiento de decenas de cajas

que han sido utilizadas por ustedes porque estaban ahí dentro eso también son hechos y eso es lo que queremos desterrar no queremos desterrar a ningún partido político democrático los partidos políticos son indispensables lo que queremos desterrar son

en euskadi durante largas décadas y ustedes lo saben perfectamente mucho mejor que yo por cierto esas son las prácticas que queremos desterrar de determinadas instituciones en beneficio de partidos políticos o de miembros destacados de esos partidos políticos eso es lo que queremos desterrar

no manipule hace aproximadamente un mes el secretario general de los populares vizcaínos denunciaba la utilización por parte del partido nacionalista vasco

esto no es nuevo esto es así existe esa realidad la utilización también por parte de los partidos políticos de determinadas empresas públicas para colocar

decenas de casos qué le contestaba por cierto el portavoz de la diputación foral

le respondía ustedes hacen lo mismo en álava esto es una práctica habitual y ustedes la conocen ya digo mucho mejor que yo y alguno me preguntaba

bien qué son las puertas giratorias y a qué nos referimos a qué nos estamos refiriendo podemos poner decenas de casos algunos ya se han puesto el señor atutxa por ejemplo ex consejero del interior con el pnv consejero

el caso del señor andoni aurrekoetxea ex senador del partido nacionalista vasco consejero de enagás

vicepresidente del país vasco y luego consejero de repsol y después presidente de kutxabank o el señor josu jon imaz consejero delegado de repsol presidente de petronor

consejera de la red eléctrica de españa hasta dos mil doce eurodiputada socialista y decenas y decenas de casos

ex cargos públicos que han sido colocados en determinadas instituciones para beneficiarles no porque fueran buenos profesionales sino porque habían pertenecido a un partido político

usted lo sabe perfectamente bien no haga tanto teatro esto es una realidad y esto es lo que

harta de estos comportamientos y es lo que nosotros hemos querido traer a debate no solamente que se clarifique el tema kutxabank sino expresar la idea de que efectivamente esa forma de comportamiento ha sido extendida en euskadi

cómo pueden ustedes negar esa realidad que el partido nacionalista vasco ha utilizado también instituciones para colocar a los suyos en decenas y decenas de empresas públicas

dirigentes del partido nacionalista vasco ex cargos públicos del partido nacionalista vasco colocados en una empresa pública o en otra para que puedan cobrar un sueldo en algunos casos por cierto sin ir a trabajar ese es el planteamiento que hemos hecho

y con esto queremos acabar no queremos acabar con los partidos políticos la moción es clara que se clarifique lo que ha ocurrido en kutxabank respeto por supuesto a la justicia y después decir estamos de acuerdo con las prácticas que se han llevado a cabo por parte de los partidos políticos estamos a favor

lo que tienen que hacer es votar a favor de la moción esto

antipolítica es lo que han hecho otros lo que han robado otros la corrupción el enchufismo el amiguismo las prebendas bankia las tarjetas black los ere el caso pujol todo eso
todo eso es la antipolítica denunciarlo no denunciarlo es hacer política eskerrik asko

señor maneiro desde luego el pp vasco nunca ha utilizado las instituciones para fines propios

y si usted tiene conocimiento de alguien le animo a que lo denuncie no nos haga el discurso mezclando aquí todo

este asunto no lo ha llevado a la fiscalía upyd este asunto no lo ha llevado a la fiscalía al juzgado el señor maneiro

ese consejo de administración que usted decía que era ese

ese consejo de administración dijo que se informe al banco de españa y al banco central europeo y ese consejo de administración presenta la denuncia en la fiscalía

otra cosa es que yo no entienda por qué luego no se persone en el juzgado pero esa es otra pero ha sido ese consejo no ha sido usted el que ha destapado esto

a mí lo más sorprendente de hoy es la intervención de bildu digo yo que podían haber elegido otro portavoz

de transparencia y de estas cosas yo lo que no puedo admitir del señor casanova

es que cite al señor basagoiti porque vuelve a su puesto de trabajo donde lo tenía hombre que volvió porque ustedes

que tengamos que venir a esta cámara en el dos mil quince a escuchar estas cosas y que el portavoz de bildu diga eso y cuando hablamos de puertas giratorias pues la suya será volver a la cárcel digo yo

porque de ahí viene y nos va a hablar de ética de moralidad

a una banda terrorista que asesina que ha asesinado que ha secuestrado que ha robado que ha cobrado

usted nos viene a hablar de ética y de moralidad creo que este parlamento está llegando a niveles

señor maneiro lo que usted escribe y lo que usted firma usted escribe el uso por parte de los partidos políticos de todas las instituciones

administraciones públicas o sector público societario para defender a través de leyes no escritas pactos secretos y prebendas sus intereses particulares y partidarios esta es una acusación que hace a todos los partidos políticos

esta es una acusación que me hace a mí y yo no se lo consiento y esta es la antipolítica

esto es todo lo contrario al progreso esto es defender la política solo para los privilegiados esto es lo que defienden las derechas rancias

y acusar a los partidos de generalizar corruptelas corrupción como usted quiera llamarlo esto es lo que usted

porque usted es un irresponsable político en esta cámara porque usted no tiene sentido de la medida

pero yo no se lo consiento yo me enfrento con usted y le llamo a usted lo que creo que usted es un irresponsable un zafio por traer aquí estos planteamientos si usted tiene un caso concreto si usted sabe algo

hágalo con fundamento político haga con fundamento probatorio

para decir aquí todo lo que se le ocurra sin ningún tipo de rigor

y obviamente yo no se lo voy a consentir los más interesados en que cuando ocurre algún caso que

o que tenga signos de corrupción que tenga excesos o que tenga abusos en nuestro partido somos los que nos dedicamos a la actividad política

con ideología y con programa con compromiso durante toda la vida en los peores tiempos y en los mejores

interesados en que estas cosas se resuelvan y que se resuelvan rápidas y que funcione la justicia

en un justiciero de poca monta que no sabe a veces ni lo que dice como ha escrito en esta iniciativa esta iniciativa es una infamia absoluta

y efectivamente la vamos a rechazar pero la vamos a rechazar

con entusiasmo porque es una patraña y una barbaridad lo que usted plantea aquí y señor casanova

ejemplos de puertas giratorias mire una puerta giratoria es entrar por el terrorismo

una puerta giratoria es entrar por el impuesto revolucionario y salir por el sueldo público usted que va a hablar usted qué va a hablar aquí de honestidad de dignidad y de puertas giratorias

su pasado lo que usted ha hecho es una vergüenza para la política y para todo eskerrik asko prieto jauna casanova jauna zurea da hitza

he hablado ya varias veces en este parlamento

una respuesta tan entusiástica como esta por lo tanto pienso que quizás más que por mi persona esta reacción

responde más a la veracidad de las cuestiones que yo he venido a aquí a plantear

se podían haber desencajado el primer día podrían haber hecho este teatrillo el primer día lo que pasa que ahora

en el cual se han visto y han visto un rostro corrupto el rostro corrupto del partido socialista obrero español y el rostro corrupto del partido popular

porque no se han molestado a entrar al fondo de la cuestión responden con la descalificación

a mí que me da la legitimidad para estar aquí no son ustedes sino una buena parte del pueblo de euskal herria

y yendo a las cuestiones serias y dejando aparte a los señores que han perdido los nervios la vergüenza y la compostura señora gorospe

pero hay que considerar o hay que poner sobre la mesa dos cuestiones más por un lado cómo se ha llegado a esos resultados porque claro

a costa de no dar crédito a las pymes de ser líder en desahucios dar un peor servicio al cliente desmantelar la obra social

entonces digamos que estoy vendiendo el coche para comprar gasolina y ese no es el objetivo de una caja el objetivo de una caja y por eso

y el banco se supone que tiene que servir a los objetivos de las cajas fundadoras

es hacer una labor social desde el terreno financiero evidentemente sin perder dinero pero evidentemente con una función social y eso es lo que se está perdiendo y ese es el problema

dos cuestiones con respecto a la cam evidentemente no es la misma situación

que el señor xabier iturbe sea vicepresidente de kutxabank con muchos esfuerzos por cierto por vuestra parte para que continúe

cuando tiene el dudoso honor de haber llevado a pérdidas a la caja de ahorros del territorio más solvente de la provincia más solvente de todo el estado español que la llevó a pérdidas y alguien habló de que la entrada de kutxa en kutxabank fue prácticamente un rescate encubierto pues bien esa persona

es xabier sagredo que era precisamente la persona a la que hacía alusión antes que simultaneaba

con su presencia en el consejo de iberdrola generación y que ahora es bueno en kutxabank yo no sé si él se podrá ubicar y sabrá si ya

en el bbb en iberdrola o en kutxabank o quizás en todo momento esté defendiendo

diferentes puestos aquí sí hay un plan para destruir las cajas de ahorro no voy a revelar ningún secreto hay un plan que no es un plan secreto es un plan que ha salido en la prensa pero no es un plan que fomente eh bildu es un plan que hasta que no se desmienta esto evidentemente todas las informaciones periodísticas tienen que ser tratadas con reservas

ser más banco y menos caja de ahorro eso son los objetivos que se plantea la actual dirección de kutxabank más riesgo menor coste laboral

desmantelar y terminar con la esencia y la finalidad social de las antiguas cajas y ese plan para destruir las cajas y convertirla en un banco al uso no es el plan de eh bildu

y eso es lo que nos preocupa y por eso nosotros queremos saber cómo se ha llegado a esta situación

es una gota más en un oceano que nos llena de preocupación

el caso de cabieces efectivamente a la gente le puede dar mucha rabia porque con la que está cayendo que a otros les enchufen así de mala manera

pero el problema grande es que se funciona en estas cajas con el objetivo por parte de algunas personas

porque haya realizado una política especialmente buena en el plan de financiación no la tiene porque ha generado confianza

y ese ser algo distinto es lo que le ha dado la posición que tiene no poner a unos tiburones financieros

economicistas porque eso es lo que puede poner en peligro a kutxabank y eso es lo que queremos evitar nosotros estamos aún creemos que estamos a tiempo de revertir la situación y de que esta comunidad siga teniendo un instrumento financiero de primer orden para responder a sus verdaderas necesidades que no es colmar el narcisismo de ejecutivos agresivos

prestar servicios a través de su obra social ese es nuestro objetivo y por eso nosotros somos los que realmente creemos que estamos defendiendo lo que es

todo esto nos preocupa toda esta deriva nos preocupa ya se están dando síntomas muy graves

pediremos que esto se investigue a fondo y que se ponga sobre la mesa todos los movimientos

la catástrofe que sería no ya la desaparición la quiebra de kutxabank eso es algo difícil sino la pérdida de su esencia e incluso su absoluta privatización y el paso a accionistas privados en ello volveremos aquí la semana que viene

si kutxabank está en la situación que está no es porque haya hecho buen negocio es porque

los miembros del consejo de administración independientemente de quién los nombre no defienden ni sus propios intereses ni los intereses de quien les ha nombrado

financiera sí señor maneiro no sé porqué usted tiene que cuestionar porque sí la actuación de los miembros del consejo de administración

continuamente usted nunca hace nada por interés de euskadi

nunca por qué usted cuestiona

a qué intereses responde y qué intereses son por los que velan los miembros del consejo de administración

para terminar como hemos dicho en nuestra primera intervención

estos hechos en conocimiento de las autoridades financieras y judiciales es claramente